y a todos en primer lugar como reflexión previa consideramos que es normal que upyd haya presentado una enmienda a la totalidad

elaborado por el partido nacionalista vasco al fin y al cabo un proyecto de presupuestos no hace sino recoger las prioridades presupuestarias y políticas

son distintas a las prioridades políticas y presupuestarias del partido nacionalista vasco somos partidos políticos distintos tenemos prioridades

entendible lógico y normal que nosotros hayamos mantenido esta enmienda a la totalidad y vayamos a defenderla en el día de hoy por lo tanto normalidad absoluta esta enmienda a la totalidad de upyd demuestra que hay alternativa

del partido nacionalista vasco hay alternativa política al partido nacionalista vasco y hay alternativa presupuestaria al partido nacionalista vasco otros se han plegado al partido nacionalista vasco pero nosotros no se nos dice desde el partido nacionalista vasco y desde el gobierno vasco que no hay otra opción que esta que es la plasmada en este proyecto de presupuesto y nosotros consideramos que esto es radicalmente falso

egin daitezkeela este proyecto de presupuesto es la base de un proyecto político y la base de unas líneas concretas de actuación a desarrollar durante el ejercicio

que no compartimos ni compartimos que se obvien las reformas modernizadoras que euskadi necesita ni compartimos las prioridades políticas y presupuestarias

proyecto de presupuestos nos encontramos ante un proyecto de presupuestos continuista conservador y defensivo

a los anteriores es un proyecto poco ambicioso y profundamente

con miles de ciudadanos vascos que a día de hoy lo están pasando ciertamente mal la pobreza se incrementa la desigualdad crece la precariedad se amplia pero al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco absolutamente igual este es un proyecto de presupuestos que consolida recortes sociales que no alcanza a cubrir las necesidades reales de los ciudadanos que no prioriza correctamente el destino del dinero público

incentivar la actividad económica y crear empleo estable digno y de calidad este es un proyecto de presupuestos que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía y que queda lejos de lo que los ciudadanos necesitan eaj eta alderdi sozialistarentzako aurrekontuak dira beren interesak

pendientes en euskadi que deberían ponerse en marcha cuanto antes lo llevamos repitiendo varios años y estamos convencidos de que si estas reformas se llevaran a cabo

más recursos públicos disponibles para atender los problemas reales de la ciudadanía más recursos públicos para el fortalecimiento del estado del bienestar más

más recursos públicos para la educación más dinero para las ayudas de emergencia social más dinero para las ayudas a la conciliación

más recursos disponibles por lo tanto para atender a los ciudadanos y para atender a sus problemas reales pero este gobierno como los anteriores se niega permanentemente a impulsar esas reformas y hablo efectivamente

del sistema tributario de la lucha contra el fraude fiscal y del sector público societario zerga sistema edo fiskalitatea zerga iruzurraren aurkako

ez da kasua en relación a la fiscalidad efectivamente se acordó una reforma fiscal a finales del año dos mil trece entre básicamente el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi con el apoyo también

del partido popular esta reforma fiscal no fue lo suficientemente ambiciosa

y no fue lo suficientemente progresiva y desde luego las competencias fiscales siguen

de los territorios históricos pero en todo caso ya digo que esa reforma fiscal se quedó corta en muchísimos asuntos por lo tanto concluimos uno

ambiciosa ni se igualó el impuesto sobre sociedades al resto del estado ni se

a las rentas del trabajo ni se ha alcanzado un impuesto de patrimonio armonizado

ni las que se han tomado han sido todo lo progresivas que deberían haber sido no se introdujo progresividad suficiente

ni en las deducciones existentes y por otro lado como decía la fiscalidad sigue decidiéndose en las juntas generales de los territorios históricos en relación a la lucha contra el fraude fiscal estamos convencidos de que

mucho más se puede hacer para luchar contra ella si se pusieran en marcha determinadas medidas adicionales tendríamos más recursos para atender los problemas reales

en el documento que le presentamos y lo único que nos ha respondido el consejero es que no es competencia del gobierno

este parlamento vasco sigue sin decidir la fiscalidad de los vascos es curioso que los partidos políticos aboguen

en las juntas generales de los territorios históricos me parece una incoherencia absoluta pero en todo caso con una reforma fiscal

y más progresiva y con una lucha más contundente contra el fraude fiscal tendríamos más recursos públicos disponibles para dedicarlos realmente a lo importante cosa parecida en relación al entramado

se posponen las medidas necesarias para racionalizar este entramado así se lo expresamos en el documento que le entregamos al gobierno y el gobierno lo único que nos

remitirnos a la ponencia de duplicidades pero se pospone la racionalización del entramado institucional y se pospone la reforma de la ley de territorios históricos en nuestra opinión sigue siendo absurdo que una comunidad

tenga cuatro parlamentos cuatro gobiernos tres diputaciones tres políticas fiscales a coordinar y doscientos cincuenta y uno municipios

lo que el gobierno vasco nos dice es que apenas nada puede hacer y que si queremos proponer algo en relación a la fusión de municipios lo hagamos a través de las enmiendas correspondientes a la ley municipal pero lo cierto es que este gobierno al elaborar esa ley municipal nada en relación a esa fusión de municipios que nosotros consideramos imprescindible para prestar mejores servicios a la ciudadanía y cosa parecida en relación

las medidas suficientes para racionalizar redimensionar o reducir drásticamente el sector público societario es decir los opacos entes fundaciones empresas públicas y semipúblicas que siguen existiendo por lo tanto si todas estas medidas se hubieran llevado a cabo y si hubiera un compromiso por parte el gobierno de llevarlos a cabo tendríamos sin duda

disponibles nosotros en nuestras enmiendas parciales hemos recogido la necesidad de que determinadas empresas públicas desaparezcan o se vean reducidas drásticamente porque algunos de los trabajos que realizan estas empresas las podría realizar la propia administración y podríamos

de coste y además proponemos la desaparición de determinados organismos que consideramos que son absolutamente innecesarios o superfluos en el día de hoy

la agencia vasca de protección de datos la autoridad vasca de competencia o euskalmet todos estos organismos lo cierto es que nos suponen un coste de más de diez millónes de euros anuales y nosotros no estamos dispuestos a dar por bueno un proyecto de presupuestos que

estos gastos innecesarios estos gastos superfluos mientras se nos repite machaconamente que no hay dinero suficiente para el fortalecimiento del estado del bienestar que no hay dinero suficiente para las ayudas de emergencia social o que no hay dinero suficiente para las ayudas la conciliación luego están por lo tanto las prioridades las prioridades de upyd son distintas a las prioridades del partido nacionalista vasco y aquí concretar se consolidan los recortes sociales es un hecho incuestionable que este proyecto de presupuestos consolida los recortes sociales

el estado del bienestar mientras se destinan millónes de euros de dinero público a actuaciones innecesarias o no prioritarias las cantidades destinadas a la educación

mientras que en dos mil nueve suponían el cinco coma tres por ciento las cantidades destinadas a la salud

suponían el cuatro coma tres por ciento por lo tanto hay un recorte evidente del estado del bienestar se consolidan recortes impulsados anteriores mientras se mantiene gasto que nosotros consideramos innecesario superfluo o en todo caso no prioritario si tenemos en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía a la agencia vasca de cooperación al desarrollo se destinan casi cuarenta millónes de euros lejos de los cincuenta coma seis millónes de euros de dos mil doce

de la ley de cooperación al desarrollo se mantienen las delegaciones en el exterior embajadas prioritarias para el nacionalismo vasco pero no para upyd

de euros el fondo de innovación que alcanzó en dos mil doce los sesenta y cinco millónes de euros se mantiene en dos mil quince en la misma cuantía que en dos mil catorce es decir treinta y siete millónes de euros además no se hace el suficiente esfuerzo presupuestario

en becas en innovación en competitividad en emprendimiento en internacionalización en tecnología en comercio en turismo mientras ya digo se mantiene gasto innecesario superfluo o improductivo las ayudas de emergencia social se incrementan respecto a dos mil catorce

la cuantía de veintiuno millónes de euros cuantía insuficiente

toda la demanda y además el gobierno prorroga por cuarto año consecutivo el recorte del siete por ciento en las prestaciones sociales que el gobierno socialista validó

para las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar se presupuestan también de manera insuficiente treinta millónes de euros que no alcanzarán la demanda real el gobierno vasco además desprecia la puesta en marcha de una política ambiciosa de vivienda pública

reflejado este hecho tanto en sus políticas como en su plasmación presupuestaria mientras tanto se destina dinero público a determinados asuntos que son innecesarios ciento cincuenta millónes de dinero público

san mamés barria para su construcción diez coma cinco millónes en este proyecto de presupuestos o se presupuestan diez millónes de euros para las a llevar a cabo en un campo de futbol en san sebastián en anoeta diez millónes de euros tres coma tres millónes presupuestados en este ejercicio ya digo mientras no se toman las medidas para luchar contra el crecimiento de la pobreza la desigualdad la precariedad no se hace el esfuerzo necesario en lo que se refiere a infraestructuras y obras en centros educativos ni en lo que se refiere al trilingüismo ni en lo que se refiere a la formación del profesorado mientras se destinan

a la euskaldunización o a la e i te be evidentemente esto también es cuestión de prioridades y nuestras prioridades políticas y presupuestarias son distintas a las prioridades del partido nacionalista vasco ciento quince millónes de euros va a destinar el gobierno vasco a la euskaldunización

un día sí y otro también que no hay dinero suficiente para atender a los ciudadanos que peor lo están pasando ciento quince millónes de euros en el año dos mil quince

como aportación del gobierno vasco esto sin contar las aportaciones presupuestarias de las distintas diputaciones forales y de los propios ayuntamientos ciento quince millónes de euros se destinan también a la e i te be una que está a día de hoy al servicio del partido nacionalista vasco del gobierno vasco y del conjunto del nacionalismo y nosotros nos oponemos claramente

a validar un proyecto de presupuestos que destina ciento quince millónes de euros a financiar las ideas del partido nacionalista vasco con

los ciudadanos nos negamos radicalmente son ciento quince millónes de euros los que se proponen destinar a la e i te be se incrementa incluso en relación

ejercicios y además se incrementa la pobreza se incrementa la desigualdad y se incrementa la precariedad

como debería a todas estas situaciones y esto evidentemente es realidad estos son datos y los datos son demoledores la pobreza se está incrementando la desigualdad se está incrementando la precariedad laboral también y hay miles de ciudadanos que lo están pasando mal y hay muchísimos ciudadanos que están viendo empeorada hay miles de ciudadanos que están peor hoy que hace un año y que hace dos y el gobierno decide no atender a esta ciudadanía como realmente merece ya digo que los datos son demoledores el cuarenta y cinco por ciento de los vascos se encuentra en situación de vulnerabilidad social casi un millón de personas que ven afectada en alguna medida su situación económica y corren el riesgo de caer en la pobreza

social quienes están en riesgo severo de exclusión y de pobreza son el dieciséis coma siete por ciento de los ciudadanos esto es

personas la pobreza infantil también se ha incrementado durante el último año y el sistema vasco de protección social ciertamente supone

al incremento de la pobreza pero en todo caso no está siendo suficiente el veintiséis por ciento de las familias en situación de pobreza real no accedió

en buena medida por cierto por no cumplir el requisito del empadronamiento mínimo de tres años y estos son datos reales y cuando nosotros planteamos

estos problemas existentes nos remite exclusivamente al sistema vasco de protección social cuando ya digo está perfectamente demostrado y a los números

que este sistema no está siendo suficiente se ha producido también un incremento de la pobreza energética la pobreza energética aquella que padecen aquellas familias incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas

al cuatro por ciento de los hogares ya en dos mil trece esta cifra aumentó hasta alcanzar

la espalda también a estos ciudadanos que lo están pasando realmente mal hay otros datos de interés que el gobierno vasco

leer de manera cuidadosa para poner en marcha las actuaciones que sean necesarias para poder

seis de cada diez parados vascos lleva un año sin empleo cuatro de cada diez parados vascos llevan dos años sin empleo la tasa de paro juvenil alcanza el cuarenta por ciento solo el nueve por ciento de los contratos o de los nuevos contratos son indefinidos

no llega a fin de mes y surge una nueva clase social ciudadanos vascos que trabajan porque tienen un empleo pero que carecen del empleo digno suficiente como para poder llegar a final de mes y digo yo estos son asuntos que deberían ser prioritarios para cualquier gobierno y también para este sin embargo el gobierno da la espalda a la resolución de estos problemas no hace

como por cierto se ha demostrado en las enmiendas que ha pactado con el partido nacionalista vasco y con su rechazo a

que realizó upyd con el documento que entregamos al gobierno vasco trescientos sesenta mil personas en euskadi viven en la exclusión social

por la falta de recursos materiales y crece la desigualdad crece claramente la desigualdad en los últimos años aquella parte de la población definida como completo bienestar se ha incrementado claramente del treinta y dos por ciento de dos mil ocho al treinta y ocho coma siete por ciento de dos mil catorce sin embargo aquella parte de la población definida como bienestar casi completo se ha reducido

y el resto de la población donde se encuentran los más necesitados se ha incrementado del veintisiete coma cinco por ciento al treinta y uno coma dos por ciento datos objetivos datos que no son de upyd datos que son del propio gobierno de las estadísticas conocemos se incrementa la desigualdad ciudadanos que estaban mal hace algunos años hoy están mucho peor y son más los que

de exclusión social estos son datos reales y no nos vale que el gobierno trate de comparar

la existente en el resto de españa no nos vale son datos que evidencian que muchos ciudadanos vascos están peor de lo que estaban hace algunos años que se incrementa la pobreza

y que se incrementa la precariedad en euskadi son datos de euskadi y por lo tanto

a todo eso y superar esta situación es atender

a sus problemas no es cuadrar las cuentas o cumplir el objetivo de déficit sino sobre todo luchar eficazmente contra la pobreza la exclusión y la desigualdad social y atender como merecen a los que tienen el gobierno nos responde negativamente a todas estas reivindicaciones que upyd ha planteado a través de ese documento a través de esta enmienda a la totalidad y a través de las enmiendas parciales nosotros no hemos planteado a diferencia de otros partidos políticos enmiendas parciales para

en concreto a las enmiendas del partido socialista no hemos presentado enmiendas clientelares hemos presentado enmiendas que tienen como objetivo solucionar

se pueden ver exactamente cuáles son enmiendas parciales

el dinero destinado a la educación al desarrollo económico y a la competitividad a la salud al empleo y a las políticas sociales ahí están

para las ayudas de emergencia social más dinero para las ayudas a la conciliación más dinero para la cooperación al desarrollo más dinero para hacer frente a la pobreza energética más dinero para

nuestras enmiendas parciales y lo que está detrás

si atendemos a cuáles han sido las enmiendas o muchas o la mayoría de las enmiendas acordadas entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

y muy fácilmente que son enmiendas claramente clientelares que no tienen otro objetivo que tratar de beneficiar a

de las enmiendas del partido socialista son totalmente clientelares ya que van a actuaciones a realizar en determinados ayuntamientos gobernados por el partido

un aumento de determinadas partidas que van directamente a determinadas fundaciones de partidos políticos y todo esto en nuestra opinión supone un ejercicio vergonzoso

presupuestaria no hay dinero para lo importante pero parece ser que sí hay dinero para atender los asuntos propios del partido socialista de euskadi sí hay dinero para decenas de asociaciones con partidas de

museos locales clubes deportivos gastronomía pasarelas bidegorris o fundaciones propias esta es la forma de hacer política del partido socialista de euskadi y del partido nacionalista vasco no hay dinero suficiente

para incrementar las ayudas a la conciliación social pero sí hay dinero para los amigos de determinados partidos

allá cada cual nosotros tenemos claras nuestras prioridades y qué es lo que pretendíamos y pretendemos con esas enmiendas parciales

también con nuestro discurso y con nuestra enmienda a la totalidad aurrekontuak kontinuistak eta kontserbadoreak dira eta

zuzenketa nos encontramos por lo tanto ante un proyecto de presupuestos continuista

y defensivo donde no se recogen novedades relevantes es un proyecto de presupuestos que consolida recortes sociales que no alcanza a cubrir las necesidades reales de los ciudadanos que no distribuye el destino del dinero público de manera acertada y que no sirve para incentivar económica y crear empleo estable digno y de calidad el gobierno vasco obvia las reformas modernizadoras que euskadi necesita y equivoca las prioridades mientras se consolidan recortes en el estado

y se mantiene insensible ante el incremento de la pobreza y la exclusión social destina millónarias a entes superfluos o a administraciones innecesarias obviando que los recursos públicos son limitados en conclusión los presupuestos del partido nacionalista vasco consolidan recortes

sociales y están plagados de duplicidades ineficiencias organismos superfluos gastos absurdos y gastos identitarios

en fin es perfectamente razonable que nosotros hayamos presentado esta enmienda a la totalidad y que por lo tanto pidamos la devolución de este proyecto de presupuestos

esaldiagaz hasten da este proyecto de presupuesto es la base de un determinado proyecto político que no compartimos

el objetivo del pnv ha sido es y será garantizar y lograr el máximo bienestar social para la ciudadanía vasca

en épocas de especiales dificultades económicas como las que estamos atravesando

implementar o adoptar medidas para la reactivación económica al objeto de que se genere empleo y de crear riqueza en el país

señor maneiro también las prioridades de la sociedad vasca como recientemente hemos podido leer en el sociómetro publicado en diciembre ahora hace muy poquitos días los problemas que realmente

son estos en primer lugar y en un ochenta y tres por ciento los ligados al mercado de trabajo en segundo lugar los problemas económicos con un veintiséis por ciento en tercer lugar con un diecinueve por ciento los políticos nosotros nuestra relación el conflicto político que no lleva en algunos casos

y que la ciudadanía percibe que lo único que sirve es para gastar energías en balde

la salud o la seguridad social por eso probablemente señor maneiro y esto le debería a usted llevar a una reflexión

con lo que son las preocupaciones los problemas y los intereses de la ciudadanía vasca por eso probablemente nosotros representamos a un partido político que tiene un amplio apoyo social mientras usted representa a un partido político que es absolutamente marginal en euskadi lo que usted una y otra vez repite

y en todas las tribunas en las que usted tiene oportunidad de hablar no son preocupaciones de la sociedad vasca

horretatik ateratzen dena usted en este apartado hace una referencia

opacos y en absoluto compartimos esa afirmación dado que usted señor maneiro si tiene interés en conocer toda la información que pueda necesitar o querer la puede encontrar en los anexos presupuestarios son instrumentos absolutamente necesarios para que el gobierno vasco pueda desarrollar su política de una manera más ágil como osakidetza

cuyos resultados seguimos sin embargo esperando esaten duzu eta harritzekoa da benetan

pero entendemos señor maneiro que quien está alentando una y mil veces al gobierno para que abandone la senda de la austeridad

para que no esté mirando la última frase que he anotado de su intervención era no importa cuadrar las cuentas y

no se puede solo pensar en cuadrar las cuentas y respetar el déficit no se puede pensar no puede ser que quienes están una y mil veces alentando

a que abandone esa senda de la austeridad y que agote el margen del déficit

una cosa lleva pareja la otra en el tema de la política fiscal sabe usted señor maneiro que estamos en lo mismo del principio modelos de país diferentes usted sería feliz llevando todo lo que en euskadi tenemos

y que nos afecta a nosotros a euskadi por lo tanto este es otro ejemplo de eso usted dice

en manos de los territorios históricos y nosotros consideramos que ese lugar donde por derecho preconstitucional le corresponde

existiera un único sistema fiscal que dependiera exclusivamente de españa hablaba también de la desarmonización como hecho habitual en euskadi y debo decirle

de vigencia del sistema fiscal lo común ha sido la harmonización lo excepcional han sido las desarmonizaciones ahora bien reconocemos

sonoras que la harmonización y que la conciliación fiscal que ha existido a lo largo de todo este tiempo y por fortuna

fuera a la vía de acuerdo y de solución de este tipo de desencuentros o desarmonizaciones que puntualmente pueden y se

eta bakarrik aipatu duzu el entramado institucional

específicamente solicitada por mandato de este pleno que se tendrán que terminar esos trabajos para que

por lógica y por respeto a lo que de aquí salga el gobierno pueda tomar determinadas medidas concretas y por otra parte la política fiscal

todo lo que se ha hecho durante esta legislatura y no hay nada más en las seis primeras páginas de su enmienda a la totalidad nada más

klaro eta hau beste bat da las delegaciones vascas en el exterior

son piezas imprescindibles para la apuesta en marcha y el desarrollo de la estrategia basque country dos mil veinte a la que el consejero gatzagaetxebarria ha aludido en su intervención

y no es ninguna obsesión nacionalista lo reconoce una sentencia del tribunal constitucional berrikuntza funtsari dagokionez

partidas destinadas a incentivar la economía y creación de empleo jarduera ekonomikoa sustatzeko ondorengo guztiak bideratzen dira

ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral diozu eusko jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu proiektuak

lan eta familia bizitza bateratzeko partidetara euskaldunización cómo no upyd tiene que hacer

euskararen sustapenean inbertitzea pertsonengan inbertitzea da lo invertido en política lingüística señor maneiro en treinta años

del presupuesto cantidades ingentes de dinero todas bien invertidas todas para responder

a lo que nos corresponde a lo que tienen derecho todas las vascas y los vascos sería deseable que pudiéramos contar incluso

muy deseable pero nunca con menos recursos e i te be otro clásico de upyd o por lo menos suyo señor maneiro

como ya nos lo ha dicho el consejero cincuenta coma tres millónes de euros y lo que es más importante

nos presentó también en comisión cuál es la actividad

que se prevé para el dos mil quince y en el ámbito de atención primaria

un cero coma siete por ciento de incremento en consultas de pediatría un cero coma dos por ciento en enfermería

se espera un incremento del cero coma tres por ciento de las consultas del tres por ciento en intervenciones quirúrgicas y del cero coma cuatro por ciento en urgencias

aurrekontu batean osasunerako no despreciemos lo que tenemos señor maneiro no despreciemos

es bueno compararse para saber cómo uno está cómo estamos en relación con los demás porque los problemas económicos porque la crisis económica nos está afectando a todos por igual pero sin embargo

y hablando de pobreza los niveles de pobreza son menores en euskadi porque el esfuerzo que el gobierno está haciendo en la lucha contra la pobreza sí debemos compararnos sabiendo en el mismo contexto económico cómo distintos entornos con distintas políticas nos estamos situando y ahí le voy a dar unos datos a pesar de efectivamente del deterioro de los indicadores de pobreza y desigualdad

de euskadi sí efectivamente no pensará que vamos a venir aquí a negar que hay un deterioro los indicadores pero vamos a ver cómo responde euskadi cómo responde el gobierno vasco a ese deterioro euskadi se mantiene en el polo de menor impacto

en dos mil catorce la tasa de pobreza grave cuarenta por ciento de la mediana en euskadi se sitúa por debajo de las cifras de la ue veintiocho

cuatro coma nueve frente a cinco coma siete y cinco coma cinco por ciento respectivamente el indicador de riesgo de pobreza

comunidad autónoma de euskadi por debajo de las cifras medias de la unión europea así el veintidós coma siete por ciento de euskadi en dos mil catorce se sitúa cerca de dos puntos por debajo del veinticuatro coma cinco por ciento que caracteriza a la ue veintiocho en dos mil trece

el coeficiente de gini sabe usted que nos sitúa en segundo lugar detrás

por tanto señor maneiro sí debemos compararnos

adversas nuestra situación y la situación

es mejor por el enorme esfuerzo que el gobierno vasco está haciendo precisamente en mantener el modelo vasco de protección social

el presupuesto del dos mil quince usted lo ha calificado como conservador que no presenta ninguna novedad es un presupuesto modesto que se adapta y acorde con los tiempos que estamos atravesando pero que responde a las áreas socialmente más relevantes

políticas sociales y reactivación económica para generar empleo y generar riqueza en euskadi finaliza usted su enmienda afirmando que el proyecto de presupuesto para la comunidad autónoma vasca sustenta un

y sí efectivamente es así es el proyecto que la ciudadanía mayoritariamente ha elegido un proyecto que es la base del programa de gobierno hecho

presidenta gracias señora gorospe por todos sus halagos en relación a esta enmienda a la totalidad de diez páginas el año pasado fueron veintiuno

ambas enmiendas a la totalidad mantienen una coherencia porqueen muchos asuntos venimos a decir básicamente lo mismo defendemos los mismos principios

ideas y tratamos de fijarnos en la realidad de euskadi cuales son los problemas reales de los vascos y también los problemas reales de las vascas

dice que nuestro proyecto político es recentralizador español y que mira a españa nuestro proyecto político es español obviamente porque somos un partido político español pero que en el parlamento vasco mira expresamente a euskadi fíjese usted en nuestra enmienda a la totalidad y fíjese usted en nuestras enmiendas parciales todas ellas tienen un objetivo común tratar de mejorar la vida de los vascos y de las vascas

y de nuestra enmienda a la totalidad usted mira a españa continuamente para tratar de compararnos en determinados asuntos nosotros miramos a euskadi

gobierno en base a sus competencias podría hacer para mejorar la vida de los vascos por lo tanto miramos claramente a euskadi y ese es

del entramado institucional vasco no del estado autonómico español

estamos hablando del sistema tributario vasco no del español del vasco estamos hablando de las cosas que se hacen aquí

estamos hablando del fraude fiscal existente en euskadi no del que existe fuera de euskadi sino del que existe aquí y qué es lo que podría hacer este gobierno también a través de sus presupuestos para corregir determinadas políticas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos o empezar a plantear

o el sector público societario pero son cosas que suceden aquí son cosas de nuestra competencia entramado institucional sistema tributario fraude fiscal

pretendida obsesión también de upyd de reducir la grasa de la administración estamos convencidos de que si estas reformas se llevaran a cabo viviríamos todos mejor los vascos viviríamos mejor si esta reforma se

si se luchara más contra el fraude fiscal no he dicho que no se haga nada sino que se podría hacer mucho más o si se reformará la fiscalidad tampoco he dicho que no se haya hecho se haya llevado a cabo ninguna reforma sino que la reforma que se planteó hace un año es insuficiente esto es

tenemos los ingresos que tenemos y yo digo que si estas reformas se llevaran a cabo

tendríamos más ingresos y además liberaríamos recursos para destinarlo a lo importante

que preocupan a los ciudadanos vascos no ha visto usted nuestras enmiendas parciales señora gorospe usted que es tan aplicada

en nuestras enmiendas parciales que es lo que nosotros proponemos proponemos incrementar

el presupuesto del departamento de educación el departamento de desarrollo económico y competitividad el departamento empleo y políticas sociales estamos hablando de millónes de euros que nosotros proponemos incrementar para atender mejor las necesidades de los ciudadanos vascos usted considera que no es un asunto importante para los ciudadanos vascos a los que representamos incrementar todas estas partidas

para plantear el incremento de las ayudas de emergencia social usted considera que esto no importa a los ciudadanos vascos usted no considera que es razonable plantear un incremento en las ayudas a la conciliación o incrementos

nosotros si nosotros pensamos que sí estas son nuestras prioridades de ahí nuestra enmienda a la totalidad de diez páginas y nuestras centenares de enmiendas parciales para corregir esa situación para plasmar que hay una alternativa al proyecto político y también al proyecto presupuestario

vasco pero nuestro objetivo es defender el mayor bienestar de los ciudadanos vascos y efectivamente nosotros pensamos que esas son las prioridades de la ciudadanía usted

con el ejercicio dos mil catorce pero es que nosotros ya en el dos mil catorce el presupuesto votamos en contra

incluso con cifras superiores a lo que plantea este proyecto de presupuestos votamos en contra con lo cual este proyecto de presupuestos también votaremos en contra pero no haga trampa lo cierto es que en los últimos años lo que he planteado yo y es objetivo es que se consolidan recortes sociales claro que se consolidan y lo destinado a asuntos como la sanidad y la educación

al ejercicio dos mil nueve sin ir más lejos efectivamente se producen decrementos por lo tanto lo que digo es que se consolidan los recortes sociales y se limita

podría incrementarse esas partidas y evidentemente están

por supuesto que sí y estas son nuestras prioridades usted habla de que las partidas que se destinan a la euskaldunización en fin que es una exageración ingentes cantidades de dinero público hombre solo trescientos cincuenta mil millónes de pesetas en treinta años

si tuviéramos más recursos le haríamos caso al señor isasi

todo lo que está señalado aquí y bastante más se podría destinar

pero es que no hay los recursos públicos son escasos son limitados

a validar un proyecto de presupuestos que introduce otros ciento quince millónes de euros a la euskaldunización mientras la pobreza

entre la ciudadanía nos negamos es cuestión de prioridades nosotros nos negamos a apoyar un proyecto de presupuestos que destina ciento quince millónes de euros

haga la campaña permanente y diaria al partido nacionalista vasco nos negamos nos negamos absolutamente evidentemente es cuestión de prioridades nos negamos a que se destinen millónes de euros al deporte profesional

ciudadanos vascos los de aquí de esto estamos hablando nos negamos millones de euros al deporte profesional y hay gente que no llega a final de mes usted habla

no hombre no de un empeoramiento sustancial de la vida de miles y miles de vascos de esto estamos hablando que hay mucha gente que está peor compare los datos no compare solo el sistema vasco de protección social con lo que se hace en el resto de españa

de la gente que está en situación de pobreza hoy y la situación

los que viven peor son más no compare con el resto de españa ha empeorado la situación de miles de vascos y ustedes nos dicen que no hay dinero para eso

para las ayudas a la conciliación no hay dinero para la educación no hay dinero para la salud

que sí se puede que es cuestión efectivamente de

evidentemente las prioridades políticas y presupuestarias del partido nacionalista vasco son distintas es evidente pero creo que nuestra enmienda a la totalidad y nuestras enmiendas parciales definen perfectamente bien cual es el objetivo de upyd

y miramos lo que ocurre en euskadi y tratamos de mejorar la vida de los ciudadanos vascos y de las ciudadanas vascas esa es nuestra obsesión y eso es lo que pretendemos nosotros con esta enmienda a la totalidad y con estas enmiendas parciales gracias

con meter en sus discursos e i te be euskaldunización delegaciones vascas entramado institucional fraude fiscal y el pnv qué malo es

con eso le vale para enmienda a la totalidad para votar en contra del pnv para decir

porque la diferencia entre nosotros y ustedes es nosotros pensamos estamos preocupados y nos ocupamos

a eso nos dedicamos y miramos a españa y miramos a francia y miramos a europa para situarnos en el entorno próximo

cómo estamos situados pero nos preocupamos y nos ocupamos de todas y cada una de los vascos esa es nuestra

mira aquí porque lo que le preocupa y lo que le ocupa está allí en madrid y en españa esa es la diferencia que ustedes y nosotros y con esas palabras ya tiene todos los discursos hechos y a esas ya le he respondido en al primera intervención por lo tanto no

no nos extenderemos sin más pero me va a dejar que le lea la décima página que usted valora mucho por su contenido de su enmienda a la totalidad por todo lo expresado solicitamos se devuelva al gobierno el proyecto presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi

muchas gracias señora presidenta nosotros este año tampoco hemos presentado enmienda a la totalidad en coherencia con los acuerdos

que llegamos con el gobierno vasco el año pasado acuerdos que propiciaban la estabilidad presupuestaria tal y como reclamaba el señor lehendakari y su partido que era bueno para todas las instituciones

en ese pacto que hicimos el año pasado nos comprometíamos a propiciar la existencia de una ley de presupuestos para este año dos mil catorce dentro de una proyección plurianual con dos prioridades una la reactivación de la economía y del empleo y dos

bien comprobamos este año que en fin para el pnv la necesidad de la estabilidad presupuestaria en las instituciones ya no es necesaria salvo que gobierne el partido nacionalista vasco y lo hemos comprobado en álava perfectamente pero para nosotros sigue siendo una necesidad presupuestaria

y nos parece bueno que las instituciones democráticas tengan

ahora bien la mayor prioridad que nosotros pactamos con el partido nacionalista vasco con el gobierno vasco hace un año por estas fechas

la creación de empleo también comprobamos que para este gobierno con estos presupuestos esta ya no es la prioridad del gobierno y de hecho después de escucharle durante treinta y dos minutos al señor consejero presentando los presupuestos la palabra empleo o desempleo

para nosotros sigue siendo la prioridad el empleo y en estos presupuestos que se nos han presentado echamos a faltar algo que nos parece evidente el señor consejero nos ha dicho y tiene razón que este año para el año que viene cuenta con más de cuatrocientos millónes de euros

de los que disponía en dos mil catorce y sin embargo nos encontramos que las previsiones de inversiones del gobierno vasco para el dos mil quince disminuyen

de las que tiene hoy previstas en su presupuesto para el dos mil catorce con lo cual es evidente que ese fomento de la inversión de la creación de empleo parece que en este presupuesto este gobierno la ha dejado de lado de hecho la previsión de inversión

y menos de la mitad que en el dos mil diez según datos del eustat y el saneamiento de las finanzas públicas

más que nada a que podemos pagar menos intereses pues gracias a que el gobierno de españa cumpliendo

toma medidas y la prima de riesgo baja de más de seiscientos a poco más de cien con lo cual nos ahorramos una serie de dinero en los intereses

echamos en falta en estos presupuestos esa inversión que reactive la creación de empleo nos parece que el saneamiento de las finanzas públicas

o de las medidas para fomento del empleo si se incrementa en cuatrocientos millónes de euros el presupuesto y baja la inversión es evidente que sube el gasto corriente capítulos primero segundo tercero y cuarto

como evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con ello hemos presentado

que mueven más de doscientos millónes de euros y evidentemente para el cambio de criterio de prioridad del presupuesto que se nos ha presentado

como dijimos al principio y como seguimos diciendo nosotros seguimos dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno vasco siempre y cuando ese acuerdo

que la inversión evidentemente sea al menos la misma que este año que ya sería poco porque por lo menos tendría que ser un veinte por ciento más de la prevista para este año con esos más de cuatrocientos millónes de euros y desde luego hay partidas en materia de bienestar social como puede ser las ayudas a las familias

que evidentemente no solo están infradotadas sino que además se prevé este año también una bajada del siete por ciento con el cual tampoco

reiteramos nuestra oferta a este gobierno si de verdad

sigue siendo la del año pasado la creación de empleo podrá contar con nosotros si es otra

presidenta señorías el proyecto de presupuestos que hoy se tramita tiene dos sensibles rectificaciones condicionadas por el partido socialista

antes de desganarlas lo primero que queremos compartir con la ciudadanía vasca es que en el año dos mil quince al igual que sucedió en el dos mil catorce

cómo su contribución fiscal es de vuelta a través de políticas públicas acordar políticas que favorezcan la existencia de un presupuesto con un gobierno y un partido

cualquiera que haya seguido nuestra actividad parlamentaria sabe que somos críticos con el gobierno en sus ingresos que lo somos por su negativa a fijar objetivos en la lucha contra el fraude fiscal en este caso con la inestimable colaboración de bildu como quedó demostrado en este parlamento

contra el fraude fiscal pero menos compromisarios somos críticos también con este gobierno en

para el año dos mil quince en el anteproyecto de gastos la primera intención presupuestaria del gabinete urkullu fue la de invertir menos

de nuestras empresas en protección social y en conciliación

los servicios públicos especialmente educación y sanidad así como cooperación con estas intenciones anteproyecto y proyecto necesitaban

si querían contar con los socialistas una rectificación ya se dio

significa mucho más que el éxito o el fracaso de un gobierno

acompañada en sus necesidades de servicios y estímulos o que quede abandonada a su suerte en esta legislatura ya hay un precedente dos mil trece fue un año sin presupuestos porque el gobierno negó el diálogo y quiso imponer los recortes

lo que no nos gustaba lo lográbamos a partir del verano del dos mil trece

de oposición a las políticas antisociales y a las políticas de exageración pero no somos oposición a los ciudadanos y ciudadanas solo por el gusto

y garantía de eficacia les diré más ojalá el partido que sustenta a este gobierno

para que no hubiera reforma fiscal el partido popular no hubieran tenido

que después han tenido que corregir porque hoy tendríamos menos deuda más políticas públicas ejecutadas más necesidades cubiertas y una posición colectiva ante la crisis menos grave señorías las razones por las que los socialistas no compartimos la devolución del presupuesto están a la vista

cuatrocientos veintitrés millónes una parte de esa mayor recaudación estimada en ciento cincuenta

para implementar políticas públicas para corregir en parte sus escasas inversiones sociales

económica empleo promoción económica sanidad educación políticas sociales y solidaridad o cooperación

condición previa para negociación que así se ha cumplido la segunda

hemos mejorado entre otras las siguientes políticas públicas hay hoy más dinero para las aes que en el año anterior y que en el proyecto de presupuestos hemos incluido por primera vez

hay más dinero para la conciliación ejercemos solidaridad efectiva con el banco de alimentos

con espacios diferentes de atención y solidaridad con las personas más necesitadas invertimos más dinero en empleo en el sector de la construcción

en los planes locales de empleo o en la investigación el desarrollo y la innovación con las aportaciones socialistas hay más recursos en educación

y la investigación apoyando a ikerbasque más dinero para intensificar el

hemos renovado y ampliado nuestro compromiso con la sanidad pública y de calidad aportando más recursos en actuaciones en el hospital universitario de álava y en biocruces

de osakidetza para garantizar el material sanitario de consumo

y sociales a la actividad comercial y a la actividad deportiva también para que no se reabra la central nuclear de garoña también para reactivar el aeropuerto de foronda

de álava arasur hemos incluido una partida para elaborar un estudio del fraude fiscal en euskadi y para que se pueda luchar mejor

la tercera razón por la que hemos devuelto los presupuestos es porque nos sentimos en el mismo barco y en la misma suerte que la mayoría de la ciudadanía vasca

y se nos puede encontrar para corregir el anteproyecto y el proyecto de presupuestos para navegar mejor y para mejorar la suerte colectiva los socialistas seguimos manteniendo una postura crítica y vigilante con el proyecto de presupuestos y con la actitud del gobierno a la vez que una postura constructiva y una alternativa útil y solidaria con la ciudadanía y con el tiempo que nos toca vivir el señor urkullu y todo su gobierno sabe que nuestro compromiso está limitado a lo acordado

vacilaciones y a veces escaso interés en ejecutar después de haberse corregido esperamos que este año tal como se han comprometido

con el acuerdo alcanzado los socialistas no nacimos para ser predicadores

de sueños y de reivindicaciones sobre todo es fácil si sabes que nadie te va a pedir cuentas por ello

lo difícil es sumar entre diferentes y defender a los más débiles
apuntalar el progreso y evitar los recortes amaitzen joan impedir
y dar pasos de avance actuar sin cálculo electoral y con alto compromiso con quienes representamos servir donde no estamos para servirnos esta es la contribución de los socialistas
a los presupuestos de la comunidad autónoma vasca eskerrik asko prieto jauna